y empezamos por el objeto que se detalla en el real decreto ley que regula esta ayuda

el programa comprende políticas activas de empleo actuaciones de intermediación laboral

con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo y una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el servicio público de empleo estatal y vinculada a la participación

de activación para el empleo y desde el objeto décimos que empezamos mal qué paradoja verdad que por quienes han desarrollado una política puramente a favor

han llevado a miles de personas a la calle que quienes han implantado una reforma laboral que no ha servido sino para precarizar la situación laboral de miles de millónes de trabajadores nos quieren hacer pensar que con esta ayuda la situación de todas esas miles de personas mejorará

pero es que además en esta ocasión les dan otra vez el palo

porque realmente serán muy pocas las personas que se puedan acoger a este programa y porque a las que se puedan acoger no se le solucionará su situación y si acaso un efecto placebo les pueda producir pero nada más

aparteko programari buruzko akordioa es un programa que no va a solucionar la trágica situación que están viviendo miles de personas y que además tan solo un porcentaje muy pequeño de personas podrán acogerse a este programa no podemos aceptar

empresarios reforma en gran medida causante de la situación actual con el único objetivo de buscar réditos electoralistas

que obstaculizan el desarrollo de nuestro modelo propio de nuestro modelo y del desarrollo de nuestras políticas activas de empleo beraz irmoki salatu egiten dugu

espainiako gobernuak comisiones obreras eta ugt sindikatuekin

una mesa para dar cobertura al mayor ataque a los derechos de las trabajadoras a cambio de migajas y prebendas no nos parece admisible

y ese ese no es nuestro modelo es más en ese modelo ante ese modelo

muchas gracias presidenta arratsalde on

el concepto de diálogo social aunque es relativamente nuevo ha adquirido una importancia señalada en los debates públicos y este que hoy tenemos aquí es una prueba de ello

desde mil novecientos ochenta y fortalecido desde mil novecientos noventa

por los cuales las autoridades de la unión europea han de consultar con los interlocutores sociales

antes de elaborar una legislación o propuestas en la esfera sociolaboral por ejemplo a finales de los noventa el mercosur declaró que la promoción del diálogo social era un objetivo principal de sus políticas la organización internacional del trabajo

que en su programa de actividades para el año dos mil dos mil uno ya planteaba que el fortalecimiento del diálogo social era uno de sus objetivos principales que se proponía los buenos resultados económicos

que han puesto en práctica una participación social eficaz que ha contribuido a concienciar al público de la oportunidad

y de empleadores en la toma de decisiones de carácter económico y social este concepto integra valores inherentes a los valores de la democracia

sea cual sea la definición de diálogo social este comprende un procedimiento tripartito empleadores trabajadores y gobierno en la formulación de políticas nacionales y locales sobre cuestiones de trabajo y de carácter social y económico

para cuestión de relaciones laborales y para la toma de decisiones de la gestión empresarial en ambos casos el diálogo social es un componente

en los estados miembros de la unión europea el diálogo social es una práctica general y bien establecida que se plantea bajo básicamente dos fórmulas

los sindicatos tienen el poder de modificar las relaciones en su día fueron capaces de derrocar al gobierno de sudáfrica por aquello del apartheid e incluso en polonia un sindicato como solidaridad fue decisivo en la de un gobierno despótico a escala europea la confederación

el término diálogo social en una acepción amplia designa a los mecanismos de consulta entre los actores implicados en la problemática del trabajo gobierno empresarios sindicatos pero no solo es una consulta es también influir ahora bien es el diálogo social

la evolución del capitalismo eufemísticamente llamado economía de mercado tiende a hacer creer que la oposición capital trabajo ha desaparecido pero esto realmente es un mito la idea de que los intereses de ambas partes convergen simplemente

lo mismo del diálogo social a fuerza de administrar conjuntamente por parte de la representación social el sistema económico se exponen los sindicatos a olvidar que su función primera es la de exigir una transformación a favor de los trabajadores

y ello implica el conflicto y la lucha social por tanto

como décimos existe una trampa nosotros entendemos que no si el diálogo es la continuación de la lucha en el terreno de la discusión y no en la confrontación pura y dura

sino establecer una relación de fuerzas que se canalizan de forma constructiva que siempre será preferible a las manifestaciones violentas es en definitiva un paso adelante en el civismo

en cambio sí es una trampa entendemos cuando se trata de debilitar la capacidad de reivindicación del mundo del trabajo

en terrenos incómodos puede ser entonces una trampa para los trabajadores a veces es difícil saber

una situación u otra pero es seguro que la presencia de la representación social en el corazón del sistema aquella que pretende acceder a la información

cuestionar el propio sistema o cuestionar ciertos planteamientos

de reactivación del empleo una trampa entonces nosotros entendemos que no en su iniciativa eh bildu propone rechazar el programa de activación para el empleo porque dice que la ayuda es escasa y su duración y objetivos de gestión son inadecuados

de acuerdo incluso ahora bien aquellas

pero que de otro modo no tendrían nos plantea un dilema si por mantener ese fuero esa compostura ese señorío

qué hacemos entendemos que hoy como ayer la sociedad y los individuos se enfrentan ante dilemas dilemas éticos

en las que perfectamente se puede hacer el discurso que usted

que quizás no está exento de razón pero entonces qué hacemos olvidamos la posibilidad o ignoramos la posibilidad de ayudar aunque sea ligeramente efímeramente pírricamente pero ayuda al fin

esas ayudas son importantes por pequeñas que sean por lo tanto ese tipo de situaciones conviene también tener en cuenta

en cuanto al diálogo social ya hemos dicho que nos parece un instrumento de vital importancia

de nuevos nichos de pobreza y desigualdad que habrá que evaluar continuamente porque este es otro de los aspectos del acuerdo que se trata de evaluar continuamente y los sindicatos que celebraban ese acuerdo son los primeros en manifestar que ahí no acaba el diálogo social ni mucho menos ahí no acaba

nuevas protecciones y por lo tanto esto no es el final de un episodio si no es simplemente una página más en definitiva

es perfectamente factible hacer un discurso como el que han hecho ustedes incluso estar de acuerdo con él sí porque hasta dónde llega la capacidad de influencia y de negociación de los sindicatos se podría alcanzar más por qué han hecho ese papel los sindicatos

para acordar una serie de medidas que como digo son

y que además lavan la cara a un ejecutivo que ha laminado derechos sociales que han cogido libertades públicas

precisamente cuando una entidad cuando una organización o cuando alguien decide hacer algo que indigno pero lo hace pensando que va a dar como resultado el beneficio de alguien de un tercero

no infrecuente hay veces que padres y madres por dar de comer a sus hijos hacen cosas indignas y en cambio no haríamos un juicio severísimo sobre ese comportamiento forzado por una situación de fuerza mayor en otras condiciones ese comportamiento sí nos parecería indigno pero cuando hay una circunstancia de esa naturaleza entonces ya el juicio no es el mismo por lo tanto pongo ese ejemplo para decir que cuando esas centrales sindicales a riesgo de parecer claudicantes y de lavar la cara de un ejecutivo auténticamente involucionista

quizás para dar una ayuda a quien realmente lo necesita sabiendo que no se satisface todas las necesidades pero algunas sí por lo tanto a veces es más heroico perder

sabiendo que con eso se logra el beneficio de alguien aunque efectivamente pueda ser tildado

se planteen pero realmente lo que está en juego no es el prestigio en este caso de las centrales sindicales que

sino la necesidad de ayudar en lo que sea posible a quien lo necesita nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

la verdad es que el congreso convalidó la nueva ayuda para parados de larga duración con el voto del partido popular del partido socialista

y de coalición canaria sin embargo siendo esto cierto pues también es cierto que

a esta medida pues prácticamente por la totalidad de los grupos por los grupos que votaron a favor de esa ayuda se calificó a esta nueva ayuda como modesta parcial cicatera insuficiente apaño remiendo cataplasma

los portavoces que tomaron la palabra en aquel debate nosotros también dijimos algunas cosas y les voy a repetir en este parlamento

que se haya logrado mediante el diálogo social que detrás de esta ayuda haya un acuerdo de organizaciones empresariales y de sindicatos y dijimos que valoramos positivamente

hace tiempo decíamos que venimos criticando la caída de la tasa de cobertura en nuestro país que venimos señalando que los parados agotaban sus prestaciones

de empleo como por la duración de la crisis por los parados que iban agotando la cobertura de ese periodo de prestaciones valoramos también positivamente y decíamos que esta ayuda se pueda compatibilizar con la percepción de un salario en un contrato por cuenta ajena porque estamos hablando de parados de larga duración

una forma de que sea menos costoso para el empresario sin que ello cobren menos y por tanto es una forma de favorecer su inserción laboral

decíamos que estamos de acuerdo con la filosofía de evaluación de las prestaciones que aquí aparece porque es algo que planteamos al inicio de la legislatura y que compartimos que es que se evalúen las prestaciones decíamos que nos parece contradictorio

la protección de los parados y que cuando hay una nueva ayuda que ha contado con el consenso social votemos negativamente y fue por esto que votamos a favor de esa iniciativa

raquítica y excesivamente escasa

también decíamos que no se puede dejar de señalar las importantes deficiencias de esta nueva ayuda esta ayuda es insuficiente en primer lugar por el número de beneficiados

son tres millónes por tanto se está beneficiando al diez por ciento de los parados

la segunda insuficiencia tiene que ver con la cuantía estamos hablando de un programa

pero es que en los presupuestos generales del estado para el dos mil quince que hace poco aprobamos

por tanto se está reponiendo la mitad de lo que se detrajo los presupuestos y la tercera insuficiencia tiene relación con la duración del programa de nuevo un programa excepcional por seis meses y preguntábamos y luego qué por eso criticábamos y decíamos que nos parecía un programa insuficiente en relación al número de beneficiarios insuficiente en relación a la cuantía insuficiente en relación a la duración más allá de que

lo que nosotros dijimos en aquel pleno es que efectivamente es una cuantía insuficiente que era lo que prácticamente dijeron todos los grupos de la oposición o mejor dicho todos los grupos

porque veíamos algún aspecto positivo ya digo menos es nada pero nos parecía y nos sigue pareciendo una medida claramente insuficiente en relación a la cuantía

y en relación al número de beneficiarios que esta nueva ayuda posibilita el grupo eh bildu nos presenta una iniciativa que no aporta demasiado una iniciativa

más negativa que positiva más para rechazar que para aportar y lo cierto es que en esta iniciativa en el primer punto se proponía denunciar el acuerdo en el segundo punto se proponía rechazar firmemente el modelo económico y social que está detrás de este tipo de programas y se proponía rechazar incluso el modelo y la propia existencia de la mesa

en positivo que está recogido en el tercer punto de esa iniciativa propone que este parlamento inste al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para fortalecer

de protección social con este punto sí estábamos de acuerdo y es lo que nosotros habíamos recogido en nuestra enmienda de totalidad también podíamos estar de acuerdo con el resto pero nos parecía interesante que en este parlamento hablemos también sobre todo

una enmienda instando al gobierno a fortalecer el sistema vasco de protección social algo que ha sido incorporado también en esa enmienda

y el grupo socialista nosotros podemos compartir lo que se dice en esa enmienda de transacción que ustedes han firmado podemos estar básicamente de acuerdo con todos los puntos podemos estar

de la reforma laboral evidentemente y a que revise el salario mínimo interprofesional y decrete la actualización sistemática del mismo esto es algo que hemos debatido y que hemos votado en otras ocasiones en este parlamento y también estamos de acuerdo en que este parlamento rechace el carácter temporal del programa extraordinario de activación

así como sus condiciones y la gestión del mismo estamos de acuerdo en que este parlamento se muestre favorable al diálogo social y estamos de acuerdo en que este parlamento al gobierno a la inclusión en las clausulas de contratación pública con empresas privadas y otras posibles medidas incluyendo aquellas referidas a la igualdad

laboral que haga uso de sus competencias para hacer esto posible y finalmente evidentemente estamos de acuerdo con instar al gobierno vasco a que fortalezca el sistema vasco de protección social

finalmente seguramente votamos a favor también de este punto y votemos a favor de la transaccional completa pero me parece que no se puede obviar que disfrutamos

vía concierto económico creo que esto al menos debe decirse y por lo tanto en fin nosotros no habríamos escrito ese texto pero en todo caso

en fin por lo menos debe decirse cuando décimos y reiteramos que el sistema vasco de protección social es un ejemplo para el resto de comunidades autónomas también deberíamos tener en cuenta el sistema de financiación que existe en españa un sistema de financiación que nos beneficia muy claramente y que nos permite

disponer de más dinero para fortalecer el sistema vasco de protección social nuestra alternativa seria una renta mínima de inserción igual en todas las comunidades autónomas a partir de la cual cada comunidad autónoma en el uso de sus competencias pudiera incrementar lógicamente con cargo a sus presupuestos para lo cual ya digo que haría falta modificar el sistema de financiación del estado y de las comunidades autónomas

hoy en eso creo que la transaccional recoge lo fundamental de lo que debe defenderse a día de hoy y por esto a pesar de que no la hemos firmado

hemos manifestado por activa y por pasiva nuestra disconformidad con el programa extraordinario de activación para el empleo puesto en marcha por el gobierno del estado el programa persigue una clara rentabilidad electoral no es casualidad que se aprobase a finales de dos mil catorce

en marcha a principios del quince con una duración máxima de seis meses demasiado cerca de las elecciones municipales y forales para no generar dudas

de la pnl cuyo contenido es muy amplio desde el rechazo al modelo económico y social

sobre un real decreto ley del estado sea el momento más adecuado para debatir sobre modelos económicos y sociales y desde el rechazo ese hasta el rechazo a la existencia de la mesa de diálogo social nuestro grupo siempre

no podemos aceptar el rechazo a la mera existencia de una mesa en la que los dos agentes de la relación laboral representantes empresariales y de los trabajadores deciden sentarse e intentar llegar a acuerdos para mejorar las relaciones laborales no entendemos ni compartimos la postura de bildu

dos rechazo al carácter temporal del programa extraordinario de activación del empleo así como a sus condiciones y gestión del mismo tres que la ayuda sea compatible con el cobro de las ayudas del sistema vasco de protección ez dugu ulertzen zergatik ez den horrela guztiz diskriminatorioa iruditzen zaigu

pero el echo de que euskadi sea solidaria y tenga un buen sistema propio de protección social no quiere decir que si se implementan medidas a nivel estatal los parados y paradas de euskadi que cumplan con los requisitos establecidos al efecto

fuera de su cobertura nos parece insistimos totalmente discriminatoria la medida además de que su gestión vulnera las competencias de la comunidad autónoma tanto respecto a las políticas activas de empleo transferidas del dos mil diez

económico vía cupo cuatro apoyo al diálogo social como fórmula eficaz

que favorezcan la creación de empleo elkarrizketa beharrezkoa da guretzat bizitzako

lan esparruan ere esan dugun bezala cinco insta al gobierno vasco a que en el ámbito de sus competencias favorezca las condiciones laborales y saláriales dignas para ello se piden cláusulas especificas en la contratación pública con empresas privadas

medidas para fortalecer el sistema vasco de protección social para garantizar

sin cobertura por desempleo unas condiciones de vida dignas

gracias señora presidenta buenas tardes a todos yo de las últimas cosas que ha dicho la señora arregi yo no lo he entendido así dice que todos los grupos de esta cámara o casi todos los grupos de esta cámara

del programa de activación de empleo yo no he entendido eso he entendido que algunos grupos votaron favorablemente pero en fin serán esos grupos los que después lo pondrán de manifiesto en la iniciativa lo primero que se señala es que estamos

del gobierno del pp y que su balance es denunciable pues bien lo primero que desde este grupo queremos hacer es negar la mayor negamos la mayor claro que ha sido una legislatura difícil aunque no les guste a algunos que sigamos recordándolo pero hay que seguir recordándolo

con datos mucho peor que los que se confesaron y ya eran malos hacía la legislatura no solo difícil sino que al comienzo de la misma pintaba como una legislatura absolutamente insoportable y quiero recordar que los primeros meses de la legislatura eran una constante sobre si había que pedir el rescate o no

hubiera supuesto en el año dos mil once cuando comenzó la legislatura del partido popular se cerraban empresas sin interrupción desaparecían las inversiones no existían siquiera perspectivas de crecimiento tres mil doscientos personas perdían su empleo cada día

tres años más tarde se ha invertido la situación se ha conseguido recuperar la confianza el crédito y por encima de todo

hemos pasado de ser el problema de europa a ser el ejemplo de europa como decíamos veníamos de una época

ese que todos recordamos y no precisamente de forma grata cuyas políticas económicas y presupuestarias fueron respaldadas por ustedes por los señores nacionalistas

partidistas y que hicieron que durante seis años se destruyese empleo y ha costado invertir esa tendencia pero en el año dos mil catorce el empleo ha crecido casi un uno por ciento el avance del empleo neto

empleos en españa por ello aunque les cueste reconocerlo gracias a la acción del gobierno se ha invertido la situación de la caída

el año dos mil catorce es el primer año desde el inicio de la crisis en el que se crea empleo y se reduce el paro

hay ciento cincuenta y seis menos parados que en el primer mes de la legislatura además

hay en este momento más contratos indefinidos que en el año dos mil once hoy tres de cada cuatro personas asalariadas tienen un contrato indefinido

en tres años como decía se ha pasado de ser un país al borde de la quiebra a convertirse en un ejemplo de recuperación en el que a día de hoy se fijan otros países de la unión europea porque es el país que más crece en toda europa y el que más empleo crea y la previsión

de este último mes hacen confiar en que va a ser así y llegar al final de la legislatura con un millón de empleos creados

conseguido dieciséis meses consecutivos de reducción de desempleo y doce meses consecutivos

interanual del número de afiliados es verdad que no todas las comunidades autónomas han evolucionado de la misma manera y desde luego el país vasco no lo ha hecho

de empleo entre cantabria y el país vasco y allí nos ponían de manifiesto cuales son los datos de cantabria y en el año dos mil catorce fue la comunidad en la que el descenso del desempleo fue mayor por el contrario aquí fuimos la única comunidad no sucedió y es que como hemos denunciado en muchas ocasiones en el país vasco no se están tomando las medidas necesarias para ayudar a la generación de empleo en cualquier caso hay que destacar que lo fundamental es que entre todos entre gobiernos

trabajemos para crear empleo que colaboremos también desde las comunidades autónomas para crear empleo en este trabajo conjunto para crear empleo el veintinueve de julio el gobierno de españa

adoptaron el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita

este acuerdo recoge la voluntad de impulsar medidas en distintos ámbitos para intensificar la evolución positiva de la economía y acelerar la creación de empleo estable y de calidad

era el diseño en colaboración con las comunidades autónomas de un programa de activación para el empleo cuyo contenido será la orientación formación recualificación y o reconocimiento de la experiencia laboral es en ese programa

cuando se gesta ese programa el objetivo del mismo sería la reinserción laboral de desempleados de larga duración con cargas familiares y con mayores dificultades de colocación

este acuerdo fue acordado el quince de diciembre con los interlocutores sociales y diseñado junto con las comunidades autónomas y es que este programa evidentemente

también de euskadi el programa es una medida de responsabilidad compartida en el que las comunidades autónomas tienen un papel clave en la orientación del desempleado sus necesidades su itinerario así como las oportunidades del entorno y tendrá que encargarse también

porque como se ha dicho aquí también ver la evolución y ver cuáles son las conclusiones de ese plan también es importante

calificaron la iniciativa como imprescindible dirigida a favorecer la vuelta al empleo de unos colectivos más golpeados por la crisis en españa

parados vascos que se pondrán beneficiar cuatro mil setecientos treinta y tres en gipuzkoa

es verdad que es un plan temporal en el que después se hará la valoración es verdad que hubiera gustado que fuera

una no deja de sorprenderse después de oír debates hoy aquí que los rigores presupuestarios valgan para algunos y no valgan para otros

el no carácter ilimitado de los fondos públicos sea para algunos un argumento y sin embargo para otros parece que los recursos públicos

ilimitados en la justificación de la proposición no de ley original se hace una serie de afirmaciones de trazo grueso que

afirmaciones de trazo grueso mayores como que se hace políticas para los ricos la absolutamente injusticia de la política

pero sobre todo choca que se hable de la acción sindical y choca sobre todo la doble vara de medir a la hora de juzgar la acción sindical y los acuerdos sindicales depende de quién sean los sindicatos o qué acuerdos sindicales se lleguen entonces

cuando son otros sindicatos u otros acuerdos a los que se llegan y no gustan entonces se denosta total y absolutamente la acción sindical eso

nos tienen acostumbrados la verdad es que este grupo siempre que en esta cámara se ha hablado de empleo siempre que hemos debatido de medidas para el empleo hemos puesto a los parados de larga duración como uno de los colectivos junto con las mujeres y los jóvenes

por eso choca que cuando hay un programa que pone a uno de esos colectivos que deben tener carácter prioritario en su punto de mira sin embargo es absolutamente rechazado por el gobierno vasco y los nacionalistas pero claro cuáles son las razones para el rechazo

las mismas de siempre hoy en vez de los martes de erkoreka hemos tenido el jueves de la señora arregi

es lo mismo es la continua alusión a la invasión competencial

se meten en mis competencias el señor erkoreka este martes en vez de la queja ha tenido el recurso porque vamos semana recurso semana queja semana recurso semana queja y entonces esta semana ha tocado

el anuncio del recurso de inconstitucionalidad contra esta medida como hay una interpelación y usted mismo ha dicho señora arregi esto es un tema que se decide en el gobierno de españa y que donde debe ser controlado es en el congreso de los diputados y en una interpelación

contestará adecuadamente y les dará los datos suficientes pero yo lo que les digo es

dejen de estar continuamente apelando a las competencias y empiecen de una vez a ejercitar las suyas a tomar medidas

por lo menos como lo está haciendo el resto de españa nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz eh bilduko ordezkaria

mahaiburu andrea bueno por partes respondiendo a la

con respecto a si nosotros también

en el congreso de los diputados por supuesto que sí que también lo hemos hecho eta gure ekimenaren helburua zehazki zein den argitzeko

crear un sistema de protección que garantice que todas las personas por el simple hecho de serlo puedan llevar una vida digna

esta iniciativa aquí para que nosotros profundicemos en ese sistema y luego

también denunciar no solamente al gobierno del partido popular sino también estos dos sindicatos porque no entendemos muy bien cómo la parte que representa a la parte social

ha hecho la figura del colaborador necesario

para aprobar este tipo de programas es decir como viene haciéndolo durante toda la legislatura el gobierno del partido popular si quería haber sacado esto lo podía haber hecho solo

hasta qué parte ha podido influir o mejorar esa migaja de programa o de condiciones en definitiva

decíamos en la primera intervención que somos conscientes de que no es la panacea

y que reconocíamos el carácter claramente insuficiente de ese acuerdo y de los contenidos del mismo

porque con lo bien que marcha españa que es el país de las maravillas ese acuerdo debiera haber alcanzado mayores contenidos pero verá

hay que optar entre el mal mayor y el mal menor casi de continuo la decisión del político es normalmente no entre lo bueno y lo malo sino entre lo malo y lo peor y la pregunta que yo les hago a ustedes es

y el mal menor respecto de las ayudas raquíticas como se ha dicho

ustedes qué eligen el mal mayor es decir que no haya ayudas

todo lo que dicen respecto de que este tipo de acuerdos disfraza y maquilla situaciones pero qué prefieren el mal mayor o el mal menor

será que con todo esto alguien pueda ser acreedor de alguna de esas ayudas eso es lo que a nosotros nos parece importante porque

al final el compromiso político sindical no es para ganar

para comprometerse y a veces hasta para mancharse efectivamente pero para dar lugar efectivamente

que no siendo los deseados son al menos parcialmente resultados y como digo es verdad que dado que la marcha de españa

esos acuerdos y como he dicho ese diálogo social no ha acabado es decir eso es un continuo yo espero que en futuras ediciones en futuros acuerdos y a la vista de que realmente las cosas parece que tienen un horizonte tan

arrancar del gobierno acuerdos más fecundos y mucho mas útiles para los derechos de los trabajadores la transacción pensaba explicarlo en este punto ha sido explicada es necesario reiterar en ello solicito a los grupos que no lo han suscrito su apoyo y por supuesto agradecer al partido nacionalista vasco su disposición al acuerdo nada más y muchas gracias

respecto al partido popular señora llanos la moción sobre el paro y el desempleo la vamos a debatir el próximo

una moción consecuencia de interpelación que ha presentado su compañero el señor damborenea por lo tanto ya tendremos tiempo de debatir sobre la misma

y tendido hoy veníamos a hablar de lo que después ha terminado haciéndolo del programa de reactivación para el empleo así que al final lo ha hecho pero nos ha estado durante mucho rato hablando de datos del paro y de lo bien que se hace en españa pero bueno hay están

y solamente por la verdad que tampoco quería entrar en este tema en exceso pero simplemente decirle que

a veces se olvida de los datos los utiliza de forma interesada porque los datos de este último febrero demuestran el mejor ritmo

respecto al estado entonces ese dato que es positivo usted lo ha obviado y durante este largo tiempo en que usted ha venido dando datos

usted los omite y eso es así y es un dato de esta misma semana por lo tanto creo que también es de justicia el decirlo de todas formas esta es una carrera a largo y yo creo que

lo que tenemos que hacer es aportar todos y que por fin consigamos

para que el número de desempleados se reduzca también es cierto usted decía que la prioridad

desde el principio los parados de larga duración y es verdad que siempre lo han mencionado en sus discursos etcétera pero lo que es curioso es que habiendo sido su prioridad desde el principio usted al finalizar la legislatura como decía la iniciativa original

esta medida a finales de diciembre del dos mil catorce con efectos en enero del dos mil quince para una duración de seis meses que justamente coinciden con las elecciones municipales y forales pues qué quiere que le diga dudamos dudamos

fin totalmente electoralista porque lo tiene y respecto al último de sus puntos que hablaba de la queja el recurso de los martes del señor erkoreka y que hoy me ha tocado a mí

no se preocupe que si ustedes no se dedican a invadir competencias de la comunidad autónoma ninguna queja al respecto ni tendremos que interponer ningún recurso ante el tribunal constitucional pero mientras ustedes no cumplan con su parte no cumplan con la ley nosotros no duden que

las competencias de esta comunidad autónoma nos plantaremos utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para

a hablar de los datos del desempleo de la evolución de los datos de empleo en españa y

él por supuesto pero es que había que había que hablar de esos datos y de la evolución de esos datos por dos motivos fundamentales uno porque se hacía una afirmación

que no era cierta en absoluto y otra porque las políticas cuándo se toman y cómo se toman

con la evolución de los datos de desempleo por cómo se recibió españa y cómo está en este momento y es que eso es así

que va de maravilla no no

cuando empezó la legislatura por supuesto pero claro que no va bien

que cuando comenzó la legislatura no es que lo diga yo no es que lo diga el partido popular es que lo dice todo el mundo es que lo dice europa es que lo dicen todos los indicadores

así eso es así que les costara reconocerlo pues mire yo comprendo yo comprendo

reconocer que ha habido un gobierno que ha sido capaz de crearlo cuesta pero bueno
isiltasuna mesedez se habla de la temporalidad de los programas isiltasuna mesedez miren señores socialistas

en vigor la duración era seis meses

y el gobierno que ha dicho que hasta que no baje la tasa de desempleo del veinte por ciento se va a mantener ese programa es el gobierno del partido popular ustedes por seis meses

que lo podíamos haber hecho solos en que quedamos si no se atiende

si se toman con los agentes sociales también en que quedamos porque ustedes hablan yo les voy a decir no son palabras mías

por lo tanto es una medida necesaria que recoge una reivindicación de las organizaciones sindicales la extensión de la protección a los desempleados ha sido una propuesta de los sindicatos desde hace años no atendida por ustedes por lo visto cuando constatamos que esta crisis minaba

es una buena iniciativa que hay que apoyar que hay que hacer seguimiento de resultados evaluar y en función de ello evaluar

y en función de ello adoptar nuevas decisiones es una parte también del acuerdo y los sindicatos vamos a exigir ese seguimiento de evaluación esto son palabras de ugt no mías palabras de ugt con un buen acuerdo claro lo que pasa que es que qué es electoralista ponerlo en marcha o ponerlo no voy a decir la frase porque en tribuna queda muy mal

pero eso sí votar porque claro si no se vota sino se vota eso no queda bien

si los descalificativos que ustedes hicieron en el congreso de los diputados

por qué no tienen entonces el coraje de votar en contra por qué por qué qué es lo electoralista

o decir vamos a apoyarlo porque no queda bien no apoyarlo pero eso sí lo vamos a poner como digo a caldo perejil

que digamos que una medida tomada por el partido popular por el gobierno del partido popular es una buena medida pues miren pues como casi todas las medidas que esta tomando este gobierno

con la amenaza del rescate ahí como casi todas estas medidas lo que ha llevado es a que la senda por la que nos estaba llevando el señor zapatero apoyado por todos ustedes en todos los presupuestos esté cambiando de rumbo

estamos hoy aquí porque hace dos semanas en la interpelación que realizamos al señor consejero de salud no alcanzamos a comprender ni el consejero fue capaz de darnos una explicación a su comportamiento en el tribunal que juzgaba

una reparación al injusto trato recibido por una aspirante la que había obtenido mejor puntuación

y que esta tuvo que recurrir a la justicia para defender sus derechos hasta que por fin efectivamente estos fueron reconocidos en sede judicial señorías y hoy el gobierno ha decidido no asumir nuestra propuesta tan simple como el cumplimiento de la sentencia

resolver y reparar de un modo inmediato el daño causado ya en diciembre del dos mil doce a la aspirante con más meritos esto lo dice

y lo dice también el juez en su sentencia que la persona que tenía más meritos para conseguir la jefatura de servicio de dermatología ha sido injustamente tratada

e hicimos el reproche correspondiente al consejero que por cierto nos contestó con la vehemencia con la que despacha todo lo que desde la oposición le planteamos

desveláramos que ya conocíamos cosa que él también sabía la existencia de la sentencia para que empezará a reconducir su actuación y lo hizo realmente forzado porque el consejero acabo diciendo que estas cosas les distraen y que él no ha venido al gobierno para eso

que es correcto en un miembro de su gobierno este respeto que tiene al parlamento porque recordemos que más allá del fallo judicial

a nombrar jefe de servicio a quien había tenido la mejor consideración objetiva esa sentencia esa misma sentencia denuncia una práctica

en ese departamento lo dice el juez la de utilizar vagas excusas para cometer injusticias y esto no es una palabra que yo está aquí recriminando al consejero lo dice el juez que la decisión de osakidetza y del consejero fue injusta

y que en este caso se había actuado con desviación de poder y además utiliza desviación de poder para pretender hacernos creer que los procesos de selección se deben paralizar cuando hay un cambio de gobierno en fin estaba en su última fase solo faltaba la elevación al director gerente del hospital de la candidata seleccionada precisamente la recurrente y que había ganado la sentencia

un acuerdo que efectivamente recogía la intención señalada y decidida por comentada

político que va a llevar este asunto de que no pretendían recurrir entonces si no se va a recurrir a instancias superiores por qué no acordar que se acate el fallo por eso digo no hemos podido acordar con el grupo que apoya al gobierno

del pp y de upyd a quienes agradecemos desde aquí la sensibilidad que han tenido y la voluntad política de mejorar la práctica de la administración porque he de reconocer que algo pasa en osakidetza miren ustedes hoy debatimos el comportamiento incorrecto de un consejero y nos enteramos que a un ex consejero del mismo partido político hoy mismo

de sección de medicina interna de cruces por ilegal en fin

mejorable y eso es lo que queremos en este caso como décimos

se supere la desviación de poder que se acate la sentencia que se resuelva el trato injustamente dado a la persona solicitada

por otro lado nos hemos encontrado con una enmienda del grupo eh bildu

cuyo primer punto nos parecía muy razonable pero el segundo no lo entendemos porque habiendo una sentencia que decide

de los dos aspirantes tiene el mejor puesto no creemos que se pueda resolver

no creo que exista ningún tribunal de selección que resuelva

de los méritos por tanto solo me queda isiltasuna mesedez

entre como hemos dicho antes upyd y el partido popular que dice lo siguiente primer punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco a ejecutar la sentencia del tribunal contencioso administrativo número tres de vitoria gasteiz

de dermatología del hospital universitario de álava el segundo punto dice el parlamento insta al gobierno vasco

a respetar siempre y escrupulosamente la independencia y autonomía de los tribunales encargados de la selección de plazas en la sanidad pública

las decisiones de los tribunales de selección y que se adopten decisiones sin fundamento o con desviación de poder nada más que

con los que no hemos podido acordar que por lo menos valoren la posibilidad de no oponerse a estas propuestas

claramente ante una manipulación en un proceso de selección selekzio

manipulazioaren aurrean gaudela y que la intención

final de un proceso de selección en relación a la jefatura de servicio

gobernuaren asmoa izan da selekzio prozedura geldiaraztea kasu honetan por eso décimos que se ha producido una intervención en un proceso motivada por criterios políticos interbentzioa arrazoi politikoengatik izan da porque esta intervención en este proceso de selección en la fase final del proceso de selección

que era impedir que se nombrara al aspirante que había obtenido más méritos en consecuencia se dictó una resolución declarando desierta

detrás de esta injerencia se escondían intereses políticos

cuando hubo un cambio de gobierno pasadas las últimas

nunca puedo justificar una actuación de estas características por eso repetimos estamos en una intromisión en toda regla

que el tribunal concluyera sus actuaciones proponiendo como jefe de servicio jefa de servicio en este caso del hospital universitario de álava a la persona que ya en la fase final del proceso de selección había obtenido mayor

en toda regla la sentencia del tribunal contencioso administrativo de vitoria gasteiz en este sentido es muy clara es contundente

de abuso de poder porque lo que se sabe es que lo que realmente se pretendía era no finalizar el proceso

a un exceso a una intromisión a una injerencia concretado como dice la sentencia en un abuso de poder no se puede suspender el proceso después de estar nombrado el tribunal de selección y ya iniciado el proceso y en concreto en su fase final la autoridad no puede influir como ha hecho en este caso en la toma de decisiones y dirigir como también hemos visto claramente que se ha hecho en este caso consideramos desde el grupo popular que se ha cometido una injusticia con el aspirante que mayor puntuación había obtenido y que tenía que haber sido jefe de servicio

porque ya existía una calificación una valoración de los dos aspirantes

uno de ellos solo faltaba señorías elevar la propuesta de la candidata que había sido más valorada y no se hizo se declaró desierta la

egin da se han vulnerado los principios de mérito capacidad y acceso a la función pública por eso

por motivaciones políticas que no ha permitido seleccionar a aquella persona a la persona que había obtenido mayor cualificación para el desempeño de esta función concreta creemos y vista la contundencia y la claridad de la sentencia del tribunal

solo cabe solicitar la ejecución de esta sentencia y que se palie la injusticia cometida en la medida obviamente de lo posible

una enmienda y tengo que decir que esta enmienda ha sido incorporada como ha dicho la señora roncal a la enmienda de transacción y por lo tanto vamos a apoyar y pedíamos claramente en el primer punto

y en el segundo punto pedíamos instábamos al gobierno vasco a impedir que se vuelvan a someter y forzar como ha sucedido en este caso las decisiones de los tribunales de selección porque en este caso concreto hemos visto como se ha forzado la decisión

en la última fase cuando ya estaban valorados los aspirantes y ya había una aspirante que tenía la mayor puntuación para haber obtenido la plaza en este caso jefa de servicio de servicio de dermatología del hospital universitario álava por lo tanto creemos que no se pueden cometer este tipo de actuaciones que estamos ante un caso claro de abuso de poder y en ese sentido exigimos también una rectificación al gobierno vasco y desde luego que este tipo de actitudes y actuaciones no se puedan producir porque no se pueden producir porque van

en la línea de flotación de los principios que deben regir cualquier proceso de selección pública de mérito igualdad concurrencia publicidad y capacidad por lo tanto señorías espero que obviamente esta enmienda

sometida a votación pero no solo eso sino que obtenga porque va a ser sometida a votación el apoyo del resto de los grupos tengo que decir que me ha sorprendido la actitud del grupo eh bildu que dice que no podemos hablar de personas pero es que cuando hay vulneraciones y se producen vulneraciones

con una persona en concreto que tenía que haber sido nombrada jefa de servicio

es que repare esa injusticia por lo tanto no veo el problema en eh bildu salvo que me den otras razones o que obedezca obviamente a otras razones de que

de poder que se ha producido en este caso concreto besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

sí gracias presidenta buenas tardes qué bien funciona todo en euskadi no hay puertas giratorias ni hay corruptelas

todo funciona maravillosamente bien noticia de hoy mismo declaran ilegal la adjudicación de la jefatura de medicina interna en cruces al exconsejero inclán la juez concluye que el proceso vulneró los requisitos de publicidad

previstos en el propio decreto que regula el sistema de provisión de puestos de trabajo en el servicio vasco de salud

del país vasco ni haber cumplido con el plazo de quince días para presentar candidaturas el asunto que nos trae hoy la señora roncal en nuestra opinión es el típico caso de caciquismo y enchufismo habitual

y donde siempre hay determinados partidos políticos que están tratando de condicionar las decisiones de la administración el consejero y el partido nacionalista vasco querían nombrar a su candidato y como había otro que tenía más puntos deciden paralizar el proceso y al final acaban designando a su candidato

y santiago se convocan diversas plazas para las jefaturas de los nuevos servicios unificados

en el caso de dermatología concurren los dos jefes de sección de txagorritxu y santiago

el cambio de gobierno el tribunal se reúne el veintiuno de diciembre de dos mil doce y cuando ya tiene una decisión la de nombrar a la doctora almeida porque tiene más puntos

la convocatoria el director del tribunal acata la orden pero deja constancia en el acta que la decisión de nombrar a dicha doctora estaba ya tomada

la convocatoria porque dice que no puede conformarse el tribunal

hacen trampa hacen la trampa de cesar a los miembros del tribunal para luego declarar

meses después la dirección del hua nombre por necesidad de urgencia y con carácter provisional jefe de servicio al doctor gonzález

que se resuelve a finales de septiembre proponiendo para la plaza a ese médico el que pretendía según todos los indicios el actual consejero

almeida le da la razón y anula la decisión en la que se declaraba desierta la plaza y acuerda qué es esta doctora la que debe ser considerada para la jefatura de servicio la sentencia es rotunda y clara y acusa a osakidetza de desviación de poder como aquí se ha dicho considera que el tribunal

rechaza la paralización del proceso y le acusa de haber cometido una grave injusticia con la persona preseleccionada para el cargo esto es lo que dice estamos por lo tanto en nuestra opinión ante un caso grave puede haber más casos como este seguro que ha habido más casos como este es una práctica habitual no lo sé si es una práctica habitual pero se han cometido determinadas injusticias contra determinadas personas para favorecer a algunos este es el asunto del que estamos hablando por lo tanto en nuestra opinión

vasco y de hecho el tribunal lo ha calificado como desviación de poder el resto del proceso ha sido un cúmulo de actuaciones para llegar al nombramiento del candidato concreto finalmente elegido y apartar a la doctora almeida que por cierto es una persona

en vitoria en fin estábamos de acuerdo con la propuesta planteada nosotros lo que hicimos fue presentar una enmienda de adicción y finalmente hemos firmado entre todos los grupos enmendantes menos eh bildu

transaccional que hemos firmado y que vamos a votar efectivamente yo tampoco entiendo la enmienda planteada por el grupo eh bildu pero en fin ellos sabrán podemos estar de acuerdo en lo que se refiere al primer punto pero lo que se recoge en este segundo punto no parece que tenga demasiado sentido

al departamento de salud que abra un diálogo con el personal implicado al objeto de resolver definitivamente los problemas surgidos en relación con el nombramiento de la jefatura del servicio

el menor sentido desde luego lo que tiene que hacerse es respetar la sentencia ejecutar la sentencia y que efectivamente los derechos vulnerados

en definitiva con esa transaccional que hemos firmado gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

ejecutivo y judicial qué significa esto que el parlamento no necesita decir que se ejecuten las sentencias tal como usted pide en su moción señora roncal las sentencias se cumplen siempre como no podía ser de otra manera

que abren veinticuatro horas al día siete días a la semana y trescientos sesenta y cinco días al año ejecutando miles de acciones diarias porque la salud no puede esperar

y todas aquellas inherentes a las relaciones laborales que son muchas qué sucede

de todas esta actividad que se genera en el ámbito de las relaciones laborales

que se produzcan algunas desavenencias que finalicen en una judicialización y que sea una instancia diferente al poder ejecutivo quien dilucide las mismas

somos incapaces de acertar en una votación que consta de presionar un botón de tres opciones

y uno blanco para la abstención pues bien señora roncal el caso que hoy nos ocupa pertenece a una situación de estas no la de presionar un botón sino la anterior este modelo de legalidad

porque señoría esta cámara representa al poder legislativo sin olvidar eso sí que también tiene la competencia de control al gobierno con esto qué le quiero decir

porque el poder judicial tiene los mecanismos suficientes para ejecutar las sentencias usted está en todos sus derechos de ejercer sus competencias que como parte del poder legislativo le corresponden pero usted está haciendo un juicio paralelo

del hospital universitario de álava respetemos los mecanismos judiciales que en torno a la misma existen

y esperaría la decisión del juez como así también se lo habíamos comunicado a la demandante que parecía estar de acuerdo pero no ha sido posible como bien hay un complemento de sentencia para ver cómo la podíamos ejecutar señora roncal por otro lado y me imagino que en contra de los deseos de la demandante usted coloca en el foco público el nombre de la demandante en su moción consecuencia de su interpelación

y usted debería de haber hecho lo mismo la señora roncal lo resume de que todo es culpa del consejero cuando se trata de un recurso

que declaró desierta la plaza de jefatura de servicios de dermatología del hospital

y de la desestimación del recurso de alzada a dicha resolución del ocho de enero del dos mil catorce la señora roncal sabe perfectamente como así lo reconoce en la interpelación al consejero que este propio consejero solo llevaba cinco días en el cargo y lo único que le transmite al director de asistencia sanitaria es que le dejen sentarse en la silla

sí señora roncal el consejero de salud colaboro con la justicia facilitándole toda la documentación obrante en su departamento sobre dicha jefatura

pero usted en sus deseos de manipular y hacer juicios paralelos en su anterior comparecencia cuestionaba que el consejero hubiera facilitado la documentación obrante y no hubiera aportado ningún instrucción escrita evidentemente porque no la había

en el mismo contexto y con la misma instrucción esa que usted insistentemente alude al consejero solamente se produjo una suspensión

el problema no esta en la instrucción orden dada por el consejero sino en el uso que la gerencia del hospital hizo de ella esto que significa por más que usted lo repita que con la misma instrucción el propio hospital

solo en un caso actuó de esa manera las otras siete de este hospital

se celebraron con normalidad y este detalle se queda en el olvido

el consejero ni ha intervenido ni intervendrá en ningún tribunal ni en ningún proceso de provisión cuya competencia la tienen las organizaciones de servicios de osakidetza por lo tanto primero

y los mecanismos que en el entorno del ámbito judicial correspondan porque creemos y trabajamos por un modelo de estado en el que la división de poderes fortalece nuestra democracia segundo respetemos la confidencialidad

que se ven inmersos en los recursos judiciales salvaguardemos su anonimato y tercero trabajemos para que desde nuestras competencias los procesos de selección

se ajusten a los principios de igualdad capacidad mérito y transparencia por todo lo cual apoyaremos la propuesta de bildu eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

señor carro las sentencias se cumplen siempre sí pero a veces a veces

osakidetza o el órgano que ha sido

que ha perdido esta sentencia recurre a una segunda instancia obligando y alargando el proceso y manteniendo la situación de injusticia más tiempo por eso hemos pedido el acatamiento de la sentencia

es que se ejecute inmediatamente que no se obligue a acudir a una segunda instancia que sabe usted que vuelve a ser otra vez cuestión de años

y claro me dice usted que ha entregado todo lo que había por escrito naturalmente los poderes fácticos nunca han mandado las órdenes por escrito siempre son verbales

al candidato al que va a ser el ejecutor y el consejero reconocido por él no solo en el parlamento conmigo en la interpelación

para pedir la paralización del tribunal naturalmente que ya no tenía que intervenir más

entonces no me diga que aquí hemos manipulado o sea el consejero hizo el acto necesario para paralizar el tribunal que fue la llamada poder

lo dice el tribunal desviación de poder es decir utilizar su nombramiento para fines diferentes

ese nombramiento desviación de poder no diga que aquí estamos manipulando porque no hay un escrito una orden escrita del consejero no hacía falta estaría bueno

vuelvo a decirle lo que deseamos y por eso se pide el cumplimiento de las sentencias para que no haya una segunda instancia que retrase y agrave aún más la situación de injusticia con la que se le ha tratado a la responsable de dermatología también que que figure el nombre de la jefa de servicio de dermatología

son públicas no son confidenciales son públicas y el nombre de esta señora

y cuando cumplan ustedes que estoy segura de que lo van a hacer

como jefe de servicio y en la intranet respecto a bildu tengo que reconocer

el primer punto es absolutamente razonable y lo que dicen en el segundo también pero oiga falta en el medio la reparación de la injusticia es que es imposible

es imposible normalizar las relaciones laborales y hacer unos acuerdos y hablar y al diálogo sino hay una reparación de la injusticia y la reparación de la injusticia significa

los grupos que han aceptado llegar a un acuerdo y como digo espero

que efectivamente ejecuten la sentencia que no vayan a la segunda instancia y que no

eta zuk badakizu ubera andrea ez dela ulertzen y al final lo que hemos visto

es que ustedes mutuamente se están salvando en el tema de e i te be eh bildu le echa una manita al partido nacionalista vasco y

se están salvando mutuamente en algunos asuntos y ustedes sabrán por qué ese intercambio de cromos

claro señor carro cuando los casos son tan alarmantes tan injustos tan claros

por motivos políticos por intereses políticos y que no lo dice el partido popular

la sentencia a la hora de hacer su intervención hay que denunciarlos y hay que traerlos a este parlamento cómo no cuando en este parlamento hemos hablado de asuntos del mundo mundial de asuntos que no tenían

con esta cámara y han conllevado un pronunciamiento de esta cámara cómo no va a llevar o no va a tener lugar un pronunciamiento

ha señalado esta sentencia creo que es muy contundente en esa conclusión ustedes nos hablan aquí

ustedes que son los primeros antes estos señores se colocaban en primera línea pero ustedes ahora últimamente

critican resoluciones judiciales claro aquellas que no les gustan pero ustedes hablan de respeto a las resoluciones judiciales tienen

judiciales pues claro que ustedes tienen que dar explicaciones como también tendrán que dar las explicaciones de cómo se ha anulado también

interna del hospital de cruces pues claro claro que habrá que dar explicaciones por qué no se nombran a las personas que resulta que tienen mayores puntuaciones en un proceso de selección

no sea nombrada y como parece ser que se nombra a una persona y una resolución que no ha sido ajustada a derecho y que se han vulnerado según también otra sentencia derechos

y mire yo no sé si tiene la sentencia o la ha leído pero es que es muy clara

por una orden verbal que él mismo calificó de absolutamente inusual excepcional cuando era conocedor que el tribunal que el mismo presidía gozaba de independencia esto lo dice la sentencia dice que ya se había pronunciado por la calificación o valoración de ambos

superior por tanto solo cabía elevar al órgano convocante la propuesta de la candidata mejor valorada que es lo que no se hizo y habrá que explicar por qué no se hizo y ahí hubo una clara intencionalidad política y por eso el tribunal

entendida esta como un uso desviado de las potestades o facultades administrativas toda vez

no se conoce pero sí se sabe que no era finalizar el proceso y nombrar a la persona seleccionada con mejores méritos

eskerrik asko legebiltzar buru andrea mire con esa orden verbal

el treinta y uno de octubre cuatro el nueve de noviembre una el veintiuno de noviembre otra el veintisiete de noviembre otra y el diez de diciembre una semana antes de que yo tomara posesión la octava eso es lo que dice el consejero que nos dijo en la intervención la del veintisiete de noviembre es la de la dermatóloga cómo es posible que si manda

paralizar y lo único que manda es que le dejen sentarse en la silla porque solamente llevaba cinco días porque no solamente están estas siete convocatorias

y me quieren decir que de una en concreto por un mal uso que ha hecho ese director gerente

pues como todos los caminos van a roma seguro que será así señora roncal leemos la sentencia sí

que el juez también ha dicho que no hay nulidad absoluta ni de pleno derecho como la parte actora había solicitado

tediosamente hizo escuchar al testigo y trataba de enseñar al juzgador efectivamente porque se quiere cumplir la sentencia señora roncal

con ese complemento de sentencia que se le ha solicitado al juez porque como comprenderá y le voy a leer

la séptima del fallo dice procedería a imponer las costas a la administración pero dado que vamos a estimar parcialmente el recurso

cuando vino finalizando la misma y estando el recurso declarado concluso y para sentencia después de dos horas y cuarenta y cinco minutos la vista

cuando un juez es capaz de establecer determinadas conductas

explicar exactamente cómo se hace la toma de posesión y lo que debería haber hecho es haber pospuesto para haberle dado esa oportunidad

porque exactamente usted podía haber dicho simplemente la jefa del servicio de dermatología

y ni tan siquiera en esta moción con secuencia de interpelación que usted ha puesto con el nombre y cuando le dije que podíamos llegar a una transacción y que había hablado

demandante que es el abogado y que me dice que estaba bastante resquemor con que usted hubiese puesto el nombre

porque no lo hacen bien y no es bueno y le vuelvo

lo más importante respetemos los fallos judiciales y los mecanismos que en el entorno del ámbito judicial correspondan porque creemos y trabajamos por un modelo de estado en el que la división de poderes fortalece nuestra democracia dos respetemos la confidencialidad

que se ven inmersos en los recursos judiciales salvaguardemos su anonimato aquí todo no vale señora roncal

se ajusten a los principios de igualdad capacidad mérito y transparencia eskerrik asko eskerrik asko carro jauna eztabaida amaituta